señora presidenta señorías me gustaría que esta moción que hemos traído hoy

y que tiene que ver con dar la voz a los que saben con aproximar la política a la ciudadanía con escuchar y atender sus peticiones

y hacer de la política un instrumento útil para la transformación de nuestra sociedad estoy segura de que todos los que en estos momentos siguen este debate aquí en la cámara y estoy segura que también el resto de los parlamentarios

ejercemos la política más allá de lo que ahora se pueda decir

que surge como saben tras el debate de la interpelación de unos días sobre el nivel emprendimiento en euskadi la interpelación que dio motivo a esta moción tiene que ver con la tasa de actividad de emprendedores en euskadi que según el informe

ocupa la más baja de españa seguramente y yo creo que en aquel momento también pudimos debatirlo

que explican esas bajas tasas de creación de empresas de número de emprendedores en euskadi

creo que esas cifras no es lo más preocupante al menos en mi opinión no es lo más preocupante lo preocupante es la evolución negativa

con la capacidad de emprender y cómo desde la gestión del gobierno vasco podemos y debemos ser más eficaces y otros asuntos y quiero decir claramente que es una realidad que existe

impresionante para generar ideas y proyectos que no se trata en este debate o por lo menos esa no es mi intención la de ofrecer datos negativos para criticar su gestión

sobre como la gestión pública y no tanto el gasto público sino la gestión pública puede y debe ser más eficaz para impulsar

en un instrumento que nosotros proponemos en esta moción que sería una ponencia para analizar este asunto con los que saben con los que están

ese es el objetivo de esta iniciativa y crear de una vez una ponencia sobre lo que importa

a nuestros ciudadanos que es nuestro desarrollo económico el paro la economía protagonizada por quienes saben

desde lo público desde la gestión y cabe preguntarse por qué una ponencia sobre autogobierno

una ponencia sobre el desarrollo económico en euskadi acaso no es uno de los principales preocupaciones de los ciudadanos no estaríamos atendiendo

preocupaciones tal y como demuestran una y otra vez las encuestas sobre las preocupaciones de los ciudadanos vascos cuáles son sus inquietudes

ideas y proyectos pero la realidad es que cuesta muchísimo que estas ideas y proyectos se conviertan en negocio y ese

entre la generación de ideas y la de negocios y muchas de esas ideas se terminan quedando en el cajón existen los

recursos públicos dedicados al emprendimiento pero es evidente que es insuficiente nosotros creemos que falta iniciativa privada e iniciativa y compromiso publico también no solo aportando dinero en presupuestos

donde quisiera detenerme pienso que la mejor manera de ayudar desde los gobiernos a los emprendedores es con una cultura clara de favorecer

en concursos obviamente dentro de un orden y me explicaré el gobierno vasco y el resto de instituciones públicas sacan a concurso

para facilitar o al menos priorizar la entrada de empresas emprendedoras eso favorece a estas mucho más que cualquier ayuda económica

sé que es un planteamiento que puede tener sus aristas

ya se hace y que aquí en euskadi también se han producido situaciones y pongo dos ejemplos

una empresa que vende unos aparatos que miden la coagulación de la sangre

es su cliente en el primer filtro les han dejado fuera en un nuevo concurso ha caducado el contrato y lo sacan a concurso

porque el tiempo del resultado de su aparato es de sesenta y dos segundos mientras que el requisito puesto es de sesenta segundos la competencia es una importante multinacional de la industria farmacéutica lo paradójico

siendo el aparato de los emprendedores vascos más barato y de aquí por contra otro caso

cuando salieron el gobierno vasco lo instaló en toda la upv siendo un producto de una categoría

esto les permitió mejorarlo y desarrollarlo y poder crecer más adelante compitiendo hoy en día a nivel mundial sin esa ayuda

con estos dos ejemplos quería remarcar la idea que trato de trasladarles es que desde la gestión pública

se pueden hacer mucho por nuestro tejido emprendedor me gustaría que a partir de los indicadores expuestos en el informe sobre emprendimiento fuéramos capaces en esta cámara de dejar de un lado nuestros

y tuviéramos la altura de miras para convocar en una ponencia

a los emprendedores a los agentes económicos a la sociedad que genera valor añadido y conoce el ecosistema a la perfección sobre el que trabajan

y compartir aprender cotejar y adaptar nuestra acción pública en beneficio común

de todos creo que no es tan difícil que es cuestión de voluntad política multiplicar los procedimientos de participación popular en el trabajo parlamentario esto ya está inventado en otros sistemas y creo que puede mejorar nuestro debate la elaboración de las leyes de las acciones

reúna las mayores voluntades posibles es evidente que la sociedad está avanzando mucho más rápido que las instituciones o que los gobiernos y como consecuencia de ello los representantes democráticos estamos mucho más presionados y exigidos

de lo cual sinceramente yo me alegro pero tenemos que ser capaces de extraer la máxima calidad de las aportaciones

para que exista una comunidad más amplia que la del mero parlamentarismo si el parlamento responde a los ciudadanos con iniciativas como esta

estoy segura de que esto contribuirá

a los ciudadanos con lo que realmente les preocupa con su día a día el aumento de la participación

entre representantes y representados por eso señorías hoy les pido que votemos a favor de crear esta ponencia en la que todos podríamos aprender

como no hay una transacción no voy a extenderme pero sí quiero explicar al menos dos cosas para qué sirve lo que hemos acordado en la transacción que agradezco a bildu y al pnv porque ha sido

parte de las tres formaciones de mucha generosidad y pensando de verdad en la solución del problema y por qué razón no podemos apoyar hoy la propuesta del partido popular aunque compartamos lógicamente la importancia del asunto del emprendimiento lo compartimos tanto que el grupo socialista recurrentemente plantea iniciativas tanto en el pleno como en la comisión como cuando se presentan los planes

la mejora de los planes y de las actuaciones porque es un tema que efectivamente sentimos

en época de crisis pero la moción de la señora quiroga no pretende actuaciones concretas para un momento

los empresarios todo aquel que lleva una empresa adelante o lleva

para esa generación de empleo y de riqueza en este momento

es seguir diagnosticando seguir hablando cuando eso ya está hecho afortunadamente estamos en un país en el que la tradición

emprendimiento autónomo tiene un recorrido muy amplio muy compartido tiene muchas carencias

tenemos que partir de lo que hay para mejorarlo cambiarlo y reforzarlo sobre todo

y es lo que venimos a proponer en la transacción que como digo hemos alcanzado tenemos un plan que está aprobado solo hace unos meses en la mitad de la legislatura y no nos podemos permitir como digo en esta crisis

lo que conocemos porque lo conocemos las personas que se endeudan para abrir una empresa las empresas que generan internamente nuevos negocios

ninguno de ellos puede esperar y como le decía es que hay un plan recién aprobado

como no contemplar medidas que se habían hecho la legislatura pasada y son fundamentales para fomentar el emprendimiento u otras que se han visto como imprescindibles nosotros las hemos presentado como resoluciones cuando se discutió el plan

para decirle al gobierno que eso tiene que incorporarlo a su trabajo por lo tanto estamos en la misma posición crítica y de ayuda a que se resuelva el problema

no es algo de pájaros y flores o algo de descripción general

que incluso han sido cuestionadas por el grupo del gobierno y que hoy son aceptadas en esta transacción por ejemplo

la falta de concreción en la financiación año por año por los programas

lo ha criticado recurrentemente el que más

transacción aparece al principio como que eso tiene que hacerlo el gobierno y el grupo que sustenta al gobierno

yo entiendo perfectamente que lo va a hacer ahí estaremos para verlo también sabemos que las nuevas empresas tienen un gran problema incluso una vez

porque necesitan asesoramiento fiscal comercial laboral

bien para todo eso hay una medida también de proveer de servicios especializados a las empresas de reciente creación que lo están pasando mal hoy que no tienen que esperar una ponencia que va a tener efecto si lo tiene la próxima legislatura

para no alargarme con actuaciones concretas de oportunidad algunas de ellas como el foro anual para fomentar el emprendimiento

ahora y sí hay dos párrafos al final de la transacción que me parecen muy importantes aparte de estas medidas uno de ellos que le exige al gobierno que cada año evalúe lo hecho y lo traiga a este parlamento y ese balance lo analizaremos todos lo cual

lo que en el plan se dice o lo que hoy aprobemos y hay otra también muy importante el sistema de emprendimiento vasco se ha conformado en gran medida

hay mucha tipología de empresas mucha diferencia territorial

que intervienen desde los ayuntamientos al gobierno pasando por las diputaciones es un sistema de alubión que se va ordenando poco a poco de distinta manera pero por eso

es fundamental y en la mesa interinstitucional esa coordinación tiene que funcionar y se lo exigimos al gobierno y tiene que existir necesariamente esa coordinación porque una respuesta en una pregunta mía a la consejera de este año dice por ejemplo

la financiación de los cinco aspectos que recoge

en los apartados de las diputaciones forales hay diputaciones que emplean diez millónes de euros como la de bizkaia pero la de álava emplea quinientos setenta y dos mil es decir la política se hace

y no puede ser que los alaveses tengan el mismo tipo de apoyo al emprendimiento que a los vizcaínos y los guipuzcoanos cuando la diferencia de inmersión es tan elevada

significa también ir dando el mismo tipo de apoyo en todos los territorios estamos hablando

crecimiento consolidación y transmisión de empresas ya digo por poner un ejemplo

la política se hace con medidas y con los presupuestos

para terminar decir que

actuaciones concretas ahora le toca al gobierno y es importante que actúe

porque el emprendimiento es una posibilidad cierta de combatir el paro pero tiene muchas dificultades la mortandad de empresas es muy alta por eso en esta transacción introducimos una medida que pretende ayudar a corregir esto basta ver que según el ine el diecisiete coma seis por ciento de las nuevas empresas desaparecen el primer año y solo sobreviven el cuarenta y dos por ciento cinco años después

pero también para comprobar si el gobierno está a la altura del desafío gracias eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

los jóvenes de entre veinte y treinta y cinco años quizás el público más mayoritario en cuanto a intención

consideren cuestiones como las siguientes la formación que se da en el sistema educativo es el aspecto más valorado entre las condiciones formales para el emprendimiento ya que un veintidós coma ocho por ciento considera que lo

o bastante otra de las cuestiones que comentan los servicios de asesoramiento al emprendimiento con un dieciocho coma seis por ciento son el segundo aspecto del entorno formal más valorado por debajo de esos dos las ayudas económicas de apoyo al emprendimiento un seis coma cuatro por ciento las medidas fiscales un cinco coma seis por ciento

un negocio un cinco coma cinco por ciento y las condiciones que ponen los bancos y cajas para dar créditos un dos coma cuatro por ciento por lo tanto podemos considerar

en cuanto a las medidas fiscales también el veintiocho coma uno por ciento considera que favorecen poco el emprendimiento el trece coma siete por ciento que no favorecen nada por lo tanto más de cuatro de cada diez personas consideran pues que las medidas fiscales aún no favorecen lo

creemos que la crisis ha provocado que los riesgos percibidos a la hora de emprender sufran una evolución muy significativa aumenta la incertidumbre relacionada con los ingresos del treinta y uno por ciento en dos mil diez al cincuenta y tres por ciento en dos mil trece y la inseguridad asociada al trabajo por cuenta propia del veinte por ciento en dos mil diez al treinta y seis por ciento en bi mila hamairu es decir la crisis

y regulares y de cierta sensación de seguridad a más crisis más deseo de seguridad más deseo de estabilidad y de ingresos regulares es decir no solamente no aumenta el deseo de trabajar por cuenta propia sino que desciende del veintiséis coma tres por ciento en dos mil diez

las principales razones que se argumentan para preferir trabajar por cuenta ajena son no tener responsabilidades

evitar el trabajo duro evitar los riesgos y gastos y disfrutar de la protección social asociada

entre las razones para preferir trabajar por cuenta propia predomina en este caso el deseo de independencia y de tomar sus propias decisiones la satisfacción personal y

muy residual en dos mil diez ejemplifica una situación en la que la crisis aboca en algunos casos a plantearse el emprendimiento como vía para lograr un empleo en que la propia persona establezca sus condiciones laborales

no es el mejor motivo para dar el paso de montar un negocio en estos momentos emprender por necesidad o por una vía innovadora también los ha habido ha habido casos aunque hay una cuestión que nos debe de transmitir esperanza como país

el porcentaje de negocios consolidados con una antigüedad superior a los tres años se duplica con respecto a dos mil doce y alcanza el cuarenta y siete por ciento así mismo

de los negocios es muy elevada el ochenta y uno coma cinco por ciento confía en la continuidad del negocio los próximos tres años como ven aún hay mucho

y debemos combinarlo por lo tanto con la industria de tamaño mediano

consideramos que el modelo de autoempleo de estructuras pequeñas empresariales en colaboración con otras y no en competencia nos dará las claves de los próximos veinte años tendremos empresas de tamaño grande y mediano sí pero la coyuntura más demanda un cambio en la cultura social de la dicotomía entre trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia la coyuntura actual demanda prestigiar y apoyar mucho más al emprendedor porque necesitamos varios miles de ellos para poder poner este país de nuevo en marcha también quiero aportar algún dato sobre los flujos de nacimiento

pertenecen al estrato hasta dos empleos con el ochenta y cinco coma cinco por ciento del total de desapariciones dista mucho del resto de tamaños siguiéndole el estrato de tres a cinco trabajadores con el nueve cinco

es por esto que no solo creemos que el acompañamiento en la puesta en marcha no solo creemos que debe darse el acompañamiento en la puesta en marcha de un negocio de una nueva empresa

su propia velocidad de crucero como la señora quiroga ha expuesto en esta tribuna había una frase que solía decir

que me encantaba sí nos miramos al espejo seguimos siendo pequeños pero sí nos comparamos ay si nos comparamos

es bastante es mucho más preocupante en este caso para el gobierno de mariano rajoy que lo que

hay que andar un camino previo es cierto y es el de diversificar los sectores productivos y generar cultura de emprendimiento en euskadi tenemos que seguir dando

hay que reconocer también que hay camino hecho por todo esto no consideramos necesaria ni oportuna la ponencia que solicita el partido popular

con el objeto de conseguir el máximo consenso coordinación y coherencia en la política de apoyo al emprendimiento dentro del ecosistema vasco el día dos de julio del año pasado dos mil trece

para el desarrollo de un sistema vasco de emprendimiento que promueve y apoya de forma eficaz y eficiente el potencial emprendedor de la sociedad vasca entre el gobierno vasco y las tres diputaciones forales a partir de ese momento se elaboró el plan interrinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora dos mil trece dos mil dieciséis una vez aprobado por el consejo de gobierno y remitido y aprobado también en este parlamento fue presentado por parte de la propia consejera públicamente y conjuntamente entre el gobierno vasco

este plan tiene un presupuesto plurianual asociado de doscientos sesenta y seis millónes de euros este ejercicio dos mil catorce el presupuesto asociado al plan

euros lo que da una muestra clara de la importancia de la apuesta por el emprendimiento en el conjunto de instituciones concernidas paralelamente se estableció la mesa interinstitucional de emprendimiento que también ha sido citada en esta tribuna

de llevar a cabo su evaluación y seguimiento esta mesa interinstitucional está formada por representantes políticos y técnicos de cuatro departamentos del gobierno vasco y las tres diputaciones forales y se reúne cada tres meses aproximadamente desde la mesa desde la propia mesa interinstitucional de emprendimiento

por representantes técnicos de las cuatro administraciones vascas así como también por diversos agentes de apoyo al emprendimiento para la correcta ejecución

se han establecido también mecanismos de participación de colectivos emprendedores que desarrolle la doble función por un lado de proponer nuevos temas a trabajar desde la propia mesa interinstitucional y hacer un contraste hacer un trabajo de contraste desarrollado

he venido teniendo dudas toda la semana en relación a qué hacer con esta moción planteada por el grupo popular y tenía también serias dudas en relación

los argumentos que cada grupo iba a plantear para en última instancia decidir mi voto que en este caso concreto

pero que en todo caso quiero argumentar y lo cierto es que

la interpelación de la señora quiroga en su momento y las respuestas del lehendakari así como los argumentos planteados por los grupos y también la enmiendas de cada uno de los grupos y la propia

mi conclusión es que ambas propuestas son perfectamente complementarias creo que ambas propuestas son complementarias tanto la moción original como la enmienda de transacción que han firmado

ambas partes han planteado buenos argumentos para defender cada una de las propuestas tanto en lo que se refiere a la moción planteando la constitución

recoge propuestas muy concretas y que plantea determinadas exigencias al gobierno lo cierto es que en aquella interpelación la señora

al lehendakari ciertos indicadores recogidos en el informe de la actividad emprendedora publicado

señora quiroga le realizaba al lehendakari una serie de preguntas y terminaba la interpelación la señora quiroga realizando una serie de reflexiones

la dependencia de la eurozona nuestra debilidad estructural en cuanto a una población demasiado envejecida nos obligan a transformar y modernizar euskadi para poder enfrentarnos con más competencia a un mundo ferozmente competitivo y señalaba que la transformación es obligada

podemos compartir el lehendakari le respondió

y tiene planes de actuación en marcha cosa que es cierto

firmó el acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de un sistema vasco de emprendimiento dos mil dieciséis con el objetivo puesto en el dos mil dieciséis y que se firmó entre el gobierno vasco y la tres diputaciones forales cosa que también

que el día veintiuno de julio de este mismo año se aprobó el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora que fue aprobado parlamento y le recordaba también la aprobación del presupuesto total asociado al plan de apoyo para el presente ejercicio dos mil catorce con una dotación de más de setenta y uno millónes de euros y a partir de ahí el propio lehendakari le recordaba a la señora quiroga una serie de datos que este informe también

no había señalado en su interpelación o en su intervención inicial y el lehendakari terminaba con una serie de reflexiones

una ponencia y nosotros ya digo que teníamos dudas en relación a la puesta en marcha de esta ponencia pero finalmente la señora quiroga decidió

así por lo tanto tenemos por un lado la propuesta de creación de ponencia y por otro lado tenemos una propuesta de transacción que recoge medidas muy concretas que nosotros consideramos muy pertinentes y que además ya digo que son

mayoritario de esta cámara a la señora quiroga

que no podemos perder el tiempo se le ha venido a decir que no podemos perder el tiempo en la creación de una ponencia e incluso

que la constitución de esta ponencia sería una especie de pérdida de tiempo sin embargo tiene razón la señora quiroga cuando dice o viene a decir que en demasiadas ocasiones perdemos demasiado tiempo

en asuntos que importan más a los ciudadanos como son la lucha contra el desempleo o fortalecer el emprendimiento y el crecimiento económico y tiene también razón en ello la señora quiroga nosotros no somos

favorables o desfavorables a la constitución de ponencias depende de para qué hay algunas ponencias que se han puesto en marcha en este parlamento cuya utilidad pues yo al menos pongo en duda y otras están realizando un gran trabajo y nosotros sin ir más lejos planteamos

que ningún grupo apoyó es decir que nosotros la constitución de una ponencia podemos considerarla útil depende para qué y

de las circunstancias en fin es por todo esto que nosotros escuchados los argumentos de las partes votaremos a favor de ambas iniciativas creo que ambas son correctas

ambas son complementarias la transaccional es más concreta pero la ponencia creo que se plantea para trabajar de manera permanente y quizás también

concluyo que el voto de upyd a pesar de que no sea decisivo en este caso

iniciativas tanto la moción para la constitución de una ponencia como a favor de la transaccional que recoge efectivamente medidas muy concretas que nosotros consideramos muy interesantes

la relación que ha hecho el señor maneiro de los antecedentes el desarrollo y demás

a recalcar el argumento que también exponía en mi primera intervención y es que creo que en este parlamento se han constituido ponencias como si fueran tótems como si fueran los grandes problemas que preocupan a los ciudadanos es decir un ciudadano se levanta todas las mañanas pensado qué pasará con el autogobierno en euskadi

o qué va a pasar con el puesto de trabajo de sus familiares o de su entorno qué va a ocurrir

porque miren yo les he escuchado a todos y cada uno de ustedes más o menos salvo en el caso

en la materia el resto se ha conformado tanto el pnv como el pse en decir que todo está inventado todo está bien las cosas van bien el diagnóstico está bien hecho las medidas son las acertadas y por tanto

y es curioso porque estamos hablando de la creación de empleo cuando yo planteo un debate sobre emprendedores no estoy hablando solo

de esas incubadoras con nuevos proyectos que veremos si salen o no salen estoy hablando de la creación de empleo

todos funcionarios como nos venía más o menos a decir el señor de bildu y que plantea las empresas

eso lo compartimos porque para poder crear empleo yo creo que una mayoría de esta cámara coincide

y lo que nos está diciendo la realidad es que las empresas no son de doscientos trabajadores como usted ha venido a decir aquí

la realidad son los datos que luego usted se ha contradicho porque primero nos ha dicho que las empresas son de doscientos y luego ha venido a decir que efectivamente el setenta y cinco creo que incluso hasta el ochenta por ciento son pequeñas y microempresas

de hasta tres trabajadores esa es la realidad y lo que nosotros tenemos que ver desde este parlamento de esta institución

usted ha hablado con emprendedores que los emprendedores no son los jóvenes de la universidad de veintidós años

los emprendedores son personas que efectivamente tienen proyectos que saben que hay líneas de negocio que se pueden abrir

y que tienen trabas es que han llegado a una transacción señor reyes gracias a la generosidad como usted dice de todos los grupos pero lo que han hecho es un corta y pega claro

y lo que vienen a decir aquí es que después de cuatro años de aprobación de la ley de emprendedores en este parlamento van a poner en funcionamiento la ventanilla

cuatro años después ustedes hablan con emprendedores ustedes les han preguntado cuáles son las trabas que encuentran no deberíamos escucharles aquí no deberíamos abrir las puertas de este parlamento a todos aquellos que son los que van a crear los ciento setenta mil puestos de trabajo porque esa es la realidad

acompañándoles no cuidándoles no necesitan que se les cuide lo que necesitan es saber que tienen a las instituciones apoyando esos proyectos acompañándoles creando riqueza creando puestos de trabajo

si van a poder desarrollar sus proyectos vitales en euskadi porque todos en la administración no

porque espero que la mayoría de este parlamento considere que los puestos de trabajo no se crean por parte de la administración sino que son las empresas que ahora les llamamos emprendedores pero que de toda la vida son los que han creado riqueza y progreso en esta tierra

debería abrir una reflexión como lo está abriendo en otras cosas en relación con el futuro de la creación

esta sociedad en los próximos años y tener un instrumento ágil y eficaz que vaya acompañando

es que van a completar el plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora con la concreción de la financiación

es que es lo que están diciendo ustedes aquí y seguramente algunas de las cosas que están aquí me parecen interesantes pero este parlamento tiene que hacer más

un instrumento abierto a todos aquellos que tienen algo que aportarnos algo que decirnos a orientarnos tenemos que tener la humildad de no venir aquí y creernos que sabemos todo sobre esto porque son ellos los que saben y tenemos que tenerla humildad de escucharles

y de tratar de que las medidas que salgan de este parlamento sean las más acertadas

puestos de trabajo y se dé una oportunidad a los jóvenes que ahora piensan que no la van a tener muchas gracias eskerrik asko quiroga

bai arratsalde on berriro bueno señora quiroga creo que no me ha entendido bien cuando

quiero un modelo económico con un estado fuerte en la prestación de servicios

la existencia de empresas públicas que presten determinados en el ámbito de la economía realicen determinados servicios empresas fuertes en sectores estratégicos

cuando llega la hora de la factura de la electricidad pues a la gente una empresa privada no le atraque que es lo que está pasando ahora o cuando tiene que echar gasolina que no le atraquen que es lo que está pasando ahora con esas maravillosas empresas privadas

con economía social y cooperativa y también con empresas privadas que tienen que hacer una aportación y que tienen un elemento de enriquecimiento de la economía entonces no solo no es un mal necesario sino que no lo he considerado ni siquiera como mal y otra cosa le tengo que puntualizar cuando usted dice si la gente se despierta o no se despierta pensando en el autogobierno

se despiertan pensando si van a tener una ope para trescientos puestos

porque ahora no se puede hacer la ope que necesita osakidetza y en otros ámbitos de la administración porque el nivel de autogobierno

cobrar las pagas o no les importa cobrar las pagas dobles cree que a los trabajadores les importa tener un convenio o no tener un convenio

entre construir una ponencia o crear una ponencia de autogobierno y las preocupaciones reales

el nivel de vida y cuestiones relacionadas con el ámbito económico de las personas con cuestiones de primera necesidad y no solo con cuestiones identitarias cuando nosotros rechazamos su propuesta no rechazamos el concepto de

en mi primera intervención rechazamos que eso se tenga que vinculizar a través de la creación de una ponencia porque consideramos que existen ya instrumentos

pero que tiene un punto de partida en estos planes y en estas medidas que ya se han tomado por tanto y por nuestra parte

hemos dejado claro que vamos a seguir manteniendo una postura activa es decir no consideramos dicho

pero sí tenemos unos primeros pasos que habrá que evaluar y en función de esa evaluación determinar qué es lo que viene después por tanto rechazamos la creación de la ponencia pero no rechazamos

a las empresas que se constituyen ni la necesidad de seguir trabajando en ese aspecto sí es cierto que nos molesta que muchas veces se haga bandera de algunas tipos de cuestiones para esconder realmente las responsabilidades y los problemas reales cuando décimos que el problema es que falta emprendimiento el problema es que falta iniciativa el problema es que se ahoga

eso es una pequeña parte del problema el problema es un problema estructural es un problema de modelo económico es un problema general mucho más grave que la cuestión del emprendimiento es un problema que tenemos que resolver dotándonos de un nuevo modelo productivo en este país

a las necesidades que tenemos y que incorpore otro tipo de factores distintos el problema no es tanto la ventanilla única o no que puede generar complicaciones técnicas

ha bajado un cuatro por ciento en este país y estamos ya por debajo de la tasa europea por tanto lo que hay que definir es un modelo con claridad un modelo económico un modelo

hay que implementar medidas que facilite que la gente que tiene ideas y que quiere hacer cosas lo pueda hacer y tenga el apoyo y el respaldo de las instituciones me ha resultado incluso sorprendente que en su primera intervención

yo traduciría como más participación popular

medidas que se pueden calificar como proteccionismo como intervencionismo por parte del estado como privilegiar a unas empresas sobre otras a mí no me parece mal a su partido sí le parece mal

está impulsando exactamente todo lo contrario desde los acuerdos internacionales que está impulsando en el parlamento europeo

aquí el otro día lo hacía referencia en la cuestión del comercio aquí echa la pelota a madrid madrid echa la pelota a bruselas aquí todo el mundo se echa la pelota pero es que en realidad sí que hay una imposición de arriba abajo

de forma más activa con la promoción de la economía local y el desarrollo de la economía local y eso en muchas veces

que se están aprobando desde su gobierno y desde la unión europea por tanto

para que las empresas sean más eficientes pero desde luego el problema no es la burocracia y el problema va mucho más allá igual que el problema tampoco es como muchas veces se dice desde la derecha

se les paga por lo que no producen no están formados hay que estudiar más no

tiene más formación de la que necesita es decir no vamos a utilizar problemas concretos como excusas

que está motivada por un fracaso de un modelo económico el modelo económico de la derecha neoliberal y que para salir de esa crisis necesitamos construir un nuevo modelo e insertar en ese nuevo modelo iniciativas para que los pequeños emprendedores puedan seguir

señora quiroga dice usted si yo he hablado con emprendedores qué gracia

es que no tiene ni idea es que eso a cualquier emprendedor que se lo enseñe

verá que está enraizado en la experiencia yo cuando hago política puedo equivocarme en las propuestas

asociaciones de empresarios estas propuestas que muchas de ellas vienen de la anterior legislatura que el gobierno este no aceptó y otras son

y este gobierno anuló y ahora tiene que reponer y otras que nacen de cuando se discutió el plan están contrastadas con el sector y si no

si no tienen dificultades de formación de fiscales comerciales

de las principales dificultades que tienen para sobrevivir aparte otras muchas que se recogen aquí es que el tiempo es el que es

mire yo no estoy de acuerdo con la ponencia porque creo que hay que actuar ahora creo que es importante discutir sobre ello

un discurso retórico sin contenido dice vaciedades tomadas de informes que tratan de

y por lo que ha dicho antes desconoce bastante el tema

qué le parece a usted una de las propuestas el foro de emprendedores a tres mil reunía tres mil personas

se hacían ahí relaciones personales comunicación de experiencias fue tan fructífero que el sector lo añora y eso usted no lo sabe no habla con ellos

que no está hecho a partir de hablar con ellos

porque yo no entiendo que una diputación como la de álava tenga diecinueve veces menos de inversión en formación de emprendedores en el dos mil trece que de las otras dos no lo entiendo para alguien que conoce tanto el sistema

para alguien que conoce tanto el sistema y que le importa tanto el emprendimiento y no entiendo que conociendo tanto el sistema

que se aprobó en este parlamento no de cuatro de hace dos no lo ha leído usted bien resulta que tardo en aprobarse hasta el dos mil doce porque el presidenta de la comisión que es del partido popular

la de la ley de emprendedores es decir que eso también es forma de hacer política para los emprendedores entonces la ponencia si saliera es una reflexión más pero yo creo honradamente que ahora lo que hay que hacer son medidas y se puede estar de acuerdo o no con ellas pero no decir que no están hechas conociendo lo que los emprendedores necesitan y si no podíamos discutirlo

todo dato que los tres grupos

hemos dicho y hemos citado en nuestras intervenciones en ningún momento he hablado yo de que parece que este gobierno da más importancia a empresas de más de doscientos trabajadores y menos a empresas de dos tres trabajadores no

porque creo que he dado datos interesantes y reales desde luego no tergiversados ni sacados de la nada yo creo que

entre la generación de empleo y lo que puede ser el emprendimiento claro que el emprendimiento es una de las herramientas que estamos y debemos de impulsar mucho más porque

claro que hay cosas por mejorar claro que has cosas por cuestionarse es que de nuevo le digo es que creo que

que hay cosas para mejorar léala por favor porque creo

de entender bien lo que en este caso en mi persona ha dicho

a explicar cuál ha sido el desarrollo del año anterior del plan y a explicar

me ha escuchado que para el año dos mil catorce el plan tiene setenta y uno millónes trescientos veintiséis mil treinta y nueve euros

que está incluida dentro del plan aunque hoy la vamos a volver a aprobar dentro del texto transaccionado entre los tres grupos es que se estableciera unas partidas concretas para cada una de las acciones en el plan una propuesta de resolución propuesta por el partido socialista

y así se aprobó como propuesta de resolución por lo tanto financiación si

grupos está claro y lo he dicho también en la primera intervención que el gobierno tiene como uno de sus objetivos estratégicos el apoyo a las empresas

emprendedores porque son las empresas no las instituciones son las empresas quienes generan empleo

este gobierno pero de verdad le ánimo a que lea las intervenciones que el resto de grupos hemos tenido y que no quiera llevar usted datos reales que los demás grupos hemos traído aquí a su debate y sí me hubiera gustado también en su segunda intervención que usted nos pudiese haber hablado incluso de araba porque le animo a que yo represento a euzko abertzaleak

explicaciones oportunas que nuestro grupo en la diputación de álava está esperando respecto al plan de empleo en aras a poder intentar una negociación

hablemos apliquémonos el cuento a nosotros mismos para luego poder dar explicaciones o exigir

buenas tardes gracias presidenta venimos a este pleno creíamos que convencidos de que todos nos tomábamos el tema de la pobreza energética en serio isiltasuna mesedez isiltasuna veníamos pensando que haber dedicado una sesión entera

era motivo suficiente para saber las carencias de nuestro sistema y sobre todo motivo suficiente para reaccionar

pero cinco días después de este pleno cinco días después de que todos los grupos presentaran propuestas e hicieran discursos sobre la necesidad de atajar de raíz las razones de la exclusión social se presentaban enmiendas a la iniciativa que hoy debatimos que contradicen todo el buenísimo desplegado en aquella sesión

del que todos somos capaces de debatir de forma insaciable pero por parte de algunos sin plantear nada concreto los socialistas nos preguntamos cómo es posible que el gobierno

plantee apoyar isiltasuna mesedez nos plantee

no sabemos cuál de los debates se han perdido no sé si en algún momento han escuchado a los ayuntamientos e incluso a los que ustedes mismos dirigen

no sé que parte no lo leyeron del informe de cáritas que habla de ciento trece mil personas en pobreza extrema y de trescientos sesenta mil vascos en riesgo de exclusión social y no sé en qué parte

ustedes no acabaron de interpretar bien lo que de verdad no sabemos es en qué tipo de euskadi vive el pnv o en qué

porque ustedes siempre hablan de españa cuando les interesa y desde luego el partido socialista de euskadi respalda todas las reclamaciones que hacen al gobierno liderado por el señor rajoy

pero nueve meses después ya no vale de nada reclamar y quedarnos únicamente en eso pero a ustedes su fondo de compromiso se les agota cuando empieza su propia responsabilidad en cuanto pasan miranda de ebro lo que sea pedir reclamar exigir al resto bien

replantearse lo nuestro y tocar el presupuesto de los departamentos liderados por ustedes siempre surge el hoy no toca pues se lo volvemos a recordar

el veintiuno de febrero hicimos una pregunta a la consejera tapia el veintisiete de febrero aprobamos la propuesta para atajar la pobreza energética también desde euskadi insisto la aprobamos

el siete de marzo hicimos una pregunta al lehendakari el ocho de abril a la consejera tapia una vez más otra vez más le preguntamos a la señora tapia el catorce de mayo al consejero darpón el veintiséis al consejero aburto el siete de noviembre

el once de noviembre una pregunta al lehendakari que además no contestó

para que sin dejar de pedir a los demás nos empecemos a mover con todo lo que está en nuestra mano pero no la respuesta reiterada de este gobierno y del partido que le apoya es pedir a rajoy y desde luego nosotros también se lo pedimos mi grupo en el congreso lo ha hecho y probablemente lo volverá a hacer la última vez

que deje de envolverse en la bandera de un sistema de protección social que no olvide hemos construido juntos y que está mostrado eficaz pero desde luego eficaz e insuficiente

se pueden seguir lanzando globos sonda se pueden promover nuevas tasas que no sabemos quién pagará se puede seguir haciendo discursos y también se puede hacer y además se debe y se tiene que hacer fíjense que ni siquiera estamos hablando de alguna nueva fórmula económica que los socialistas tampoco descartamos

tanto que se miran en cataluña y viajan allí para lo que quieren y allí funciona un sistema de mediación a través de algo muy parecido a lo que los vascos llamamos kontsumobide allí quien no puede pagar por una razón sobrevenida lo comunica a su organismo de consumo y este media ante las empresas energéticas para impedir el corte de suministro

fácil sencillo y sin coste económico adicional cito cataluña para que vea que no tenemos reparos en ver iniciativas buenas con independencia de quién gobierne en ese lugar

o por no citar a los ayuntamientos que a propuesta nuestra y sorprendentemente con el apoyo del partido nacionalista vasco han adoptado medidas para que no se corte el suministro del agua en estos casos pero ustedes dicen que no

de exclusión social seguro que serán menos el pnv desconoce la realidad

y nosotros nos ofrecemos incluso a trabajar con ustedes para eliminar esas exclusiones que sean injustas

pero hoy veintisiete de noviembre hay quienes han perdido alguna fuente de ingresos cobran salarios más reducidos y no tienen la mínima capacidad de hacer frente a un imprevisto

eso ocurre hoy en euskadi y aquí en euskadi tenemos instrumentos para resolverlo o para liarlo

y quienes siempre deben actuar miran para otro lado una vez más el gobierno vasco hace que el problema esté en el tejado de rajoy

y volverán a algún micrófono a decir que ustedes tienen sensibilidad y que son el gobierno de los ciudadanos díganselo a las organizaciones que están haciendo la labor de mediación que ustedes no hacen

a los voluntarios que están pagando facturas de familias vascas que desde luego no son pocas

que con lo que hay ya vale ni vale ni llega ni alcanza

están haciendo el discurso que no corresponde con la realidad como algún otro partido político de esta cámara

una enmienda que los socialistas entendemos irreprochable y que desde luego para nosotros no tiene ningún problema salvo un detalle

y aunque no nos parecía el punto determinante de esta iniciativa original hemos incluido el punto tal cual presentó el partido popular

por lo tanto entendemos que no habrá una negativa por parte del grupo popular al apoyo de la transacción y otra cosa sorprendente

en contra este año en febrero y en noviembre proponga medidas que no forman parte de la solución sino que se sumarán a la serie de medidas que muchas veces se aprueban en debates pero que no van a algún lado y también desde luego sorprendente es que por qué se ha votado hasta ahora que no se adopten medidas ya dos veces como digo

por qué se olvida a dos terceras partes de los perceptores de la rgi que no son pensionistas

por qué se olvida a tantos vitorianos y vascos con sueldos míseros y contratos precarios gracias a la reforma laboral de un partido concreto y que también tienen dificultades para pagar sus facturas

cómo es posible que se sigan lanzando propuestas que desconocen la realidad de miles de ciudadanos entendemos que ya está bien de toda esta demagogia

pero entre las cosas que se votaron por unanimidad el siete de noviembre estuvo una propuesta del partido socialista para reforzar nuestro sistema de protección y salvarlo de intereses partidistas

un incremento de un cuatrocientos por ciento de los delitos energéticos según el último informe de la fiscalía de las familias que se enganchan de forma ilegal a otras tomas de luz para poder alumbrar y calentar sus hogares

detrás de todo esto está la realidad el banco de alimentos emprende estos días una nueva campaña de recogida masiva de comida

se ocupan de tanta gente a la que no estamos llegando con suficiencia

dejemos de taparnos los ojos dejemos de buscarnos en los titulares dejemos de escudarnos en responsabilidades ajenas todo eso sí pero sobre todo demos hoy una respuesta

seguiremos hablando de todo lo demás debemos seguir haciéndolo pero debemos atender lo urgente sin pensar únicamente en las próximas elecciones

por nuestra parte si no vemos esa respuesta seguiremos insistiendo como ya lo hicimos en otras ocasiones hasta conseguir llevar al gobierno al redil en el que tenían que estar ya conseguimos hacer cambiar de opinión al gobierno para que compensara a las rentas bajas por el prepago farmacéutico no querían pero efectivamente

les costó hicimos campaña lo planteamos en iniciativas políticas y conseguimos

no esperen más con la pobreza energética porque muchos vascos desde luego no pueden esperar

con el grupo eh bildu en el que se recoge tres puntos que planteábamos nosotros y hemos incorporado el último punto que planteaba el grupo popular de forma íntegra entendemos que el grupo nacionalista vasco no firma puesto que sus únicas reclamaciones eran dirigidas hacia el gobierno de españa

que el gobierno vasco empezara a hacer algo entendemos que nueve meses

es suficiente el invierno está encima y aquí hay que empezar a tomar medidas creemos que no es una iniciativa que se pueda votar de una forma tajante en contra puesto que esta el bienestar de los ciudadanos en manos hoy de esta cámara

y únicamente no sabemos qué va a hacer el señor maneiro que una vez más usted es determinante en la votación

y no se pueden poner intereses partidistas por encima del objetivo que persigue el ciudadano

garantizar que su calidad de vida sea mejor creo que eso nos corresponde a los políticos debemos estar por encima de nuestras siglas sobre todos cuando tiene que ver

por encima de lo que dicen las siglas de nuestro partido y esto nos toca a todos

y otras cosas aquí por lo tanto señor maneiro piense que en su responsabilidad también estará

muchas gracias señora presidenta señorías de todas las pobrezas que

quizás por ser la más contemporánea pero también por ser una de las más trágicas la pobreza energética está

que genera alarma social quizás tener que tomar la decisión de priorizar en los gastos

de una unidad convivencial y tener que acabar decidiendo no se enciende la calefacción para poder llegar a fin de mes o para poder ayudar a otros miembros de la familia es una decisión demasiado

entre todos nosotros cuando sucede aquí en muchísimos hogares de euskadi sin duda alguna la pobreza energética debe

esta cámara y también sin duda alguna se pueden tomar decisiones en los dos ámbitos en las dos variables que

a la pobreza energética se pueden tener y se pueden adoptar medidas que afecten a la reducción de los costes de esas facturas energéticas del gas y la luz principalmente o se puede también afectar a la renta disponible a los ingresos que tienen esas familias o esas unidades convivenciales

cualquiera de las dos maneras de actuar es francamente útil

o mejorar la renta disponible de esas familias es sin duda una oportunidad para acabar con la pobreza energética en la propuesta que hemos

afectar a la que sin duda es una medida más estructural la medida de hacer posible que los costes energéticos sean menores

especialmente de los edificios residenciales donde habitan muchas de las personas que sufren de pobreza energética para conseguir que esos edificios esas viviendas consuman menos porque son eficientemente

en el consumo de la energía por tanto con reducir la factura energética de esos hogares ese es el sentido de nuestra propuesta que hoy se ha traído a esta cámara pero no puedo pasar por alto

que es y es absolutamente útil el hacer una referencia a lo que afecta a los ingresos

la señora rojo a quien en primer lugar quiero agradecer la incorporación de nuestra enmienda al texto transaccional que han

decía algunas cosas con las que tampoco puedo estar más de acuerdo decía de algunos

si es para pedir a rajoy y también de otros en el sentido de que es necesario

a la mejora de la renta disponible a los ingresos que es

y más inmediata más a corto plazo de solventar la pobreza energética se hace referencia en esa transaccional a un sistema

para permitir que aquellas familias que tienen esa necesidad puedan obtener un ingreso adicional vía esas ayudas de emergencia social para pagar la factura energética

el pnv y el gobierno vasco ha sido francamente claro en esto y en otros puntos hay algunas frases que esgrimen con toda tranquilidad que es

no y punto y en ese sentido

que tiene roja también es pero es más roja que roja en este caso tiene que comprender que de la misma manera que el pnv ha dicho no y punto

aunque sean vox populi aunque sea evidente su necesidad de mejora también han dicho no y punto a incrementar suficientemente de acuerdo a las necesidades oportunas las partidas sufragan las ayudas de emergencia social por tanto ustedes

que tener en cuenta tienen que tener presente que esta medida las que ustedes proponen en el ámbito de mejorar la renta disponible a las familias

se choca con un muro que es el muro del gobierno vasco es el muro del grupo nacionalista que ha dicho no y punto a mejorar la capacidad de sufragar vía ayudas de emergencia social a estas persona y por lo tanto mejorar la renta disponible

y esta es la cuestión que me gustaría a colación sacar aunque no está recogida directamente en nuestra enmienda a la totalidad hay otra fórmula mucho más inmediata para garantizar al menos en muchos de los casos que afecta a la pobreza energética el que exista un ingreso adicional

depende de para quién en este caso para el gobierno vasco son unas ayudas que no están basadas en un derecho subjetivo de manera que

y allá cada uno que aguante como pueda sin embargo en la renta de garantía de ingresos sí se reconoce por ley la necesariedad de cubrir esas ayudas sociales durante todo el año

hemos hecho una propuesta y la quiero introducir en el día de hoy a colación de lo que ustedes dicen y es precisamente la posibilidad teniendo en cuenta que una de las principales bolsas de pobreza energética desgraciadamente en euskadi son muchísimas personas mayores muchísimos pensionistas que están con una pensión pequeña tratando de conseguir mantener sus costes vitales en su propio hogar y además con esa pensión

sufragar gastos de otros miembros de la unidad familiar en ocasiones para evitar desahucios en su entorno próximo o ayudar y colaborar en los gastos de sus familias lo tenemos muy sencillo el gobierno no necesita de una modificación legislativa para

semana en el consejo de gobierno modificar el decreto que establece cuáles son los máximos a los que cualquier pensionista tiene acceso y por tanto también

yo estoy de acuerdo con que las pensiones es una competencia nacional y

de lo que se hace o se deja de hacer y si es suficiente o no las políticas en materia de sostenimiento de las pensiones y estoy dispuesto a hacer al autocritica que sea necesaria lo digo desde ahora

o evidentemente muy pragmático y me parece esencial que

que es la propia renta de garantía de ingresos una herramienta que es inmediata que se puede poner en práctica mañana o pasado mañana sabiendo con certeza que

y que padecen pobreza energética podrían dejar de padecerlo simplemente si este parlamento fuerza al gobierno vasco a que modifique ese decreto para que esas

una media de cincuenta euros al año que es incluso menos del coste energético medio de muchísimas familias pero si el parlamento vasco toma una posición firme de exigencia al gobierno vasco y al grupo que lo apoya para que de forma inmediata

en ese decreto que se puede modificar cuando el gobierno establezca se cambie ese límite de lo que fijan las pensiones más bajas que tienen derecho a un complemento

hemos solucionado la mitad del problema o una buena parte del problema porque volviendo a estar de acuerdo con usted señora rojo en que para

y de rentas disponibles lo que hay que trabajar como recoge su enmienda transaccional es en las medidas para conseguir

pero y mientras tanto qué pasa todos los meses con miles de hogares

aquí en euskadi se puede albergar una medida inmediata y eficaz para que esas familias especialmente los que tienen una pobreza energética todavía mucho más débil que son las personas mayores puedan ver

porque no pedir exigir forzar al gobierno vasco a que con los recursos que ahora mismo que ellos mismos reconocen que se producen o que se destinan

el propio consejero aburto para sufragar las políticas sociales sin subir los impuestos como pide el pnv se puede

un incremento de esas pensiones más bajas de muchos mayores que sufren pobreza energética es una decisión que corresponde al gobierno vasco y que se puede aplicar mañana o pasado mañana no hay que esperar a hacer estudios ni informes ni realizar

nosotros hemos propuesto ese debate hoy no está literalmente recogido nuestra transacción en nuestra enmienda a la totalidad pero naturalmente viene a colación porque las ayudas a emergencia social

no duran todo el año especialmente se agotan en los meses de septiembre y que pasa en octubre en noviembre en diciembre con todas esas personas

qué respuesta se da desde esos grupos que cuando se acaban las ayudas de emergencia social

esa es la respuesta que pretendemos yo no creo que sea la respuesta idónea y por eso

en esa medida no obstante insisto agradezco sinceramente la incorporación

andrea arratsalde on guztioi hace escasamente veinte días el siete de noviembre

monográfico sobre la pobreza

que se aprobó sobre pobreza energética fue la resolución la cuarenta y dos que decía

directamente que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que establezca una política integral de lucha contra la pobreza en el ámbito familiar

jóvenes mujeres mayores pobreza energética etcétera y eso

es una política integral de lucha contra la pobreza y dentro lógicamente está la pobreza energética y su enmienda señora rojo

que decía que en este sentido y en cumplimiento del mandato parlamentario el pasado febrero el parlamento insta al gobierno vasco a que en tanto el gobierno de españa no asuma la responsabilidad de obligar a las empresas energéticas

establezca las medidas que sean necesarias para impedir que a ningún ciudadano se le pueda cortar la luz el agua o el gas si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas en especial en épocas de mayor demanda salió negativo se voto en contra hace exactamente veinte días si estamos buscando consensos ahora mismo precisamente ayer

sobre la pobreza energética siete puntos los últimos cuatro puntos son nuestra enmienda transaccional de hoy mañana gracias a la ocurrencia del señor maroto

pague a esos pensionistas un poquitín más cuando es una vergüenza que tengamos pensiones de trescientos cincuenta o cuatrocientos euros pues es una vergüenza que tengamos que ser desde aquí los que tengamos que complementar

sea el culpable de esa situación pida en madrid y aumente esta historia existe un amplio consenso a la hora de identificar tres factores como las principales causas de la pobreza energética ingresos económicos escasos

y los elevados precios de la energía cómo combate el gobierno de iñigo urkullu la pobreza energética vasca incidiendo también en estos tres factores tanto en el dos mil catorce como en el dos mil quince primero cómo incidirá el primer factor los ingresos económicos escasos de las familias vascas

incluyendo ciento cincuenta millónes de euros adicionales en dos mil quince a partidas sociales como ayudas a la conciliación cooperación ayudas de emergencia social políticas de empleo y formación

créale a su grupo parlamentario que es el que lo ha dicho y además de estos ciento cincuenta millónes de euros gracias a su grupo parlamentario vamos a contar con otros treinta y cinco millónes más para cuestiones evidentemente sociales y segundo lógicamente creando empleo el gobierno vasco destinará en dos mil quince mil doscientos millónes a inversión

contribuyendo a reactivar la economía del país vasco y hacer que la actividad industrial recupere el peso perdido en la economía de euskadi

al periodo anterior a la crisis por lo tanto

que son los ingresos económicos escasos de las familias vascas primero aumentando los recursos de nuestro modelo de protección social que lleva más de dos décadas funcionando en euskadi y segundo

segundo factor determinante de la pobreza energética la baja eficiencia energética de las viviendas cómo incidirá en esta baja

como lo hizo en dos mil catorce con ayudas mejorando la eficiencia energética del parque de viviendas y reduciendo el consumo de energía

para la calefacción en nuestros hogares de euskadi es el gas canalizado

del consumo en calefacción por mejoras estructurales reformando las viviendas anteriores al dos mil siete hasta el momento los estudios realizados en edificios de distinta antigüedad señalan que las cubiertas seguidas de las ventanas y las fachadas son los elementos estructurales con mayor potencial de ahorro todos estos cambios deben ser entendidos en un contexto en el que las administraciones han llevado

con el objetivo de reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas ayudadas como puede ser de las campañas de concienciación las ayudas a la renovación de las viviendas o sus componentes

luego el punto cuatro de su enmienda transaccional y tanto la enmienda del partido popular es algo que este gobierno ya lo viene haciendo

y siguen adelante dos proyectos de investigación y desarrollo tenemos también el programa pyme de visesa que coordina un proyecto que engloba catorce socios de cuatro países

la demanda energética a los edificios de más de un treinta por ciento mediante la introducción de innovadores criterios bioclimáticos y de eficiencia energética

incluir lo que son la inspección técnica de edificios que se incluirá en el presupuesto protegible

y el tercer factor de la pobreza energética son los elevados precios de la energía y cómo se va a incidir

y como las juntas generales de álava sí que han entendido esta transaccional y han recogido estos puntos

y cuando todo esto no es posible seguir aportando recursos como gobierno a la inversión y a nuestro modelo de protección social

como recomienda la comisión europea a españa que ya le ha tenido que llamar la atención la comisión europea a españa

ni se les ocurrió hacer el bono social de gas sabiendo que incluso nuestras familias vascas más de un cincuenta y cinco por ciento utilizan el gas natural como para

en calefacción se utiliza fundamentalmente gas canalizado aquí en el país vasco un cincuenta y cinco por ciento seguido de la electricidad un veintidós por ciento y un gasóleo un trece por ciento ya disponemos del bono social de la electricidad en dos mil trece

es necesario este bono social del gas también lo hemos escuchado en las noticias de ayer del de que parece ser que ya están estudiando y por fin parece ser que va a ser así esperemos señor maroto que sea así

también jubilados la comisión europea recomienda a españa que exista una autentica tarifa social de la energía que basada en la renta de los usuarios

segundo el parlamento vasco insta al gobierno de españa a establecer ese suelo social reconocido como derecho vital

para ello desarrollará la creación de la ley de medidas para prevenir la pobreza energética tercero el parlamento vasco insta al gobierno de españa a procurar un gran acuerdo sobre el modelo energético de españa

autonomía energética seguridad del suministro viabilidad y competitividad económica

de estos cuatros puntos este sí que va dirigido al gobierno vasco y no a españa

para el gobierno vasco y le ponemos tareas cuarto el parlamento vasco insta

reconocido como derecho vital para dar solución a las situaciones de pobre energética en el ejercicio de la capacidad de autogobierno siga

y agua y siga fomentando los programas para mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas en euskadi para lograr erradicar la pobreza energética y para acabar ya no los decía el propio lehendakari sobre la impresión en protección social

bien y creo que este parlamento también lo ha interiorizado y cuando hace veinte días aprobó en este pleno monográfico

a finales del año dos mil trece en el congreso de los diputados votamos a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de izquierda plural para instar al gobierno de españa a tomar medidas para hacer frente

y el pasado día veintisiete de febrero en este parlamento votamos también a favor de una iniciativa del grupo socialista a pesar de haber presentado una enmienda

a que en tanto el gobierno de españa no asuma esta responsabilidad en el ejercicio de la capacidad de autogobierno establezca las medidas que sean necesarias para impedir que a ningún ciudadano

en situación demostrable de no poder atender sus facturas en especial en las épocas de mayor demanda texto que el grupo socialista no recuerda en la justificación de la iniciativa del hoy esto el día veintisiete de febrero y el gobierno vasco ha incumplido este mandato parlamentario pero en todo caso upyd votó a favor de esa propuesta

siete de noviembre durante el pleno monográfico sobre pobreza y lucha contra el paro upyd planteó una propuesta de resolución pidiendo

energética llegamos a una transaccional con el grupo socialista pero esta transaccional firmada con el grupo socialista no salió adelante porque así lo decidieron

el partido popular y eh bildu pero nosotros hicimos ese esfuerzo de firmar una transaccional con el grupo socialista no salió porque el resto de grupos votó en contra aportaré algunos datos que ya

recordé durante ese pleno monográfico

el cuarenta y cinco coma tres por ciento de los vascos se encuentra en situación de vulnerabilidad social solo el treinta y ocho coma uno por ciento de la población vasca no se ha visto afectada económicamente mientras quienes están en riesgo severo de exclusión y de pobreza son el diecisiete coma seis por ciento de los ciudadanos esto es unas ciento trece mil personas

este informe de que los hogares con más riesgos de caer en la pobreza si se prolonga la actual situación económica son aquellos donde viven menores los recortes de los servicios públicos han hecho según este informe que dos de cada diez personas se encuentren afectadas por la exclusión sanitaria en lo referido

y de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada la encuesta revela también que cuatro de cada diez hogares vascos ha tenido que reducir los gastos destinados a alimentación los datos por lo tanto son los que son y queda perfectamente evidenciado que la pobreza la desigualdad la precariedad laboral

en euskadi y que por lo tanto este gobierno tiene que centrarse en resolver principalmente estos problemas y los grupos parlamentarios tenemos que hacer todo lo posible para

a este gobierno a que cumpla esta serie de mandatos parlamentarios cada uno con su número de parlamentarios cada uno con su responsabilidad

que muchas veces no se cumplen a través de otras medidas a través por ejemplo

presupuestaria y decíamos en aquel pleno monográfico que es posible que se nos diga que la situación de euskadi es mejor que la situación del resto de españa y siendo esto cierto tampoco podemos obviar que la situación en el país vasco ha empeorado en los últimos años y que en todo caso muchos miles de ciudadanos que lo están pasando mal más allá del sistema vasco de protección social hay miles de vascos que padecen pobreza

en julio de dos mil trece el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno vasco hizo públicos también los datos recogidos en el primer estudio monográfico realizado en euskadi sobre pobreza infantil y los datos son los que son

en ese pleno monográfico en diciembre de dos mil doce la encuesta de pobreza y desigualdades sociales ya había revelado que la crisis había duplicado el número de familias vascas sin recursos suficientes para atender a corto plazo sus gastos habituales

de bi mila zortzi es decir las cosas han empeorado en los últimos años y especialmente

meses además recordábamos hace menos de un mes en este pleno monográfico que se ha producido en este último año un incremento de la llamada pobreza energética efectivamente tal como se ha dicho la pobreza energética existe y a día de hoy

a la energía doméstica la pobreza energética aquella que padecen aquellas familias incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas afectaba en euskadi en dos mil doce al cuatro por ciento de los hogares lo que se traducía

hace algunos meses ya hablábamos de noventa mil afectados

y presentamos varias propuestas de resolución para instar al gobierno vasco a presentar distintos planes un plan contra la pobreza que incluyera medidas concretas contra la pobreza infantil e instábamos también al gobierno vasco

de la pobreza energética y alcanzamos tal como decía antes una transaccional que se votó y que la mayoría de este parlamento el partido nacionalista vasco el partido popular y eh bildu rechazaron esta propuesta de transacción debatida aquí hace

porque hace dos días con motivo de la negociación presupuestaria

utiliza cada partido político la negociación presupuestaria nosotros hace dos días entregamos al gobierno vasco un documento con veintiuno medidas concretas veintiuno condiciones que nosotros planteábamos para aprobar los presupuestos de este gobierno entre estas medidas está en marcha de medidas concretas para hacer frente a la pobreza energética

o mañana para decidir si finalmente presentamos nuestra correspondiente enmienda de totalidad pero quiero decir con esto que nosotros cuando negociamos unos presupuestos con este gobierno

al gobierno y planteamos condiciones por supuesto teniendo en cuenta que somos un solo parlamentario pero en todo caso pensamos que es nuestra obligación hacerlo y hablar de medidas concretas obviamente el sistema vasco de protección social supone un dique de contención al incremento de la pobreza pero en todo caso no está siendo

ojalá estas medidas que nosotros hemos planteado ya que alguno veo que sonríe pudiera ser planteada por grupos que efectivamente

veremos qué es lo qué ocurre en los próximos días y si efectivamente todos los partidos políticos anteponen los intereses de los ciudadanos a los intereses de sus propios

dos mil catorce estamos hablando de pobreza en el conjunto de españa estamos hablando de pobreza en euskadi estamos hablando de pobreza infantil

estamos hablando de pobreza energética estamos hablando de gente que pasa frio en su casa estamos hablando

o paga la comida de sus hijos o paga otras necesidades básicas y fundamentales nosotros en fin no éramos muy partidarios

en general pero en todo caso hay que reconocer que el propio consejo económico y social europeo ha introducido este concepto de pobreza energética todos estos datos señalan que hay que tomar medidas y que este gobierno el gobierno autonómico vasco medidas si quisiera tiene que elegir cuáles son las medidas que aprueba en esos presupuestos nosotros le hemos planteado algunas un plan contra la pobreza un plan contra la pobreza infantil incremento de las aes incremento de la rgi medidas específicas para contra la pobreza energética en conclusión ya digo vistos los datos relativos al desempleo a la precariedad laboral a la pobreza a la pobreza infantil y a la pobreza energética nosotros volvemos a exigir al gobierno que haga algo más que decir que tenemos un buen sistema

porque este sistema de protección social siendo bueno no está siendo suficiente para llegar a todos los ciudadanos que necesitan recursos para llegar de mes y por lo tanto se lo volvemos a exigir tal como lo hemos hecho en otras ocasiones que tome medidas

a la pobreza energética gracias eskerrik asko maneiro jauna

empezaré por rectificar porque dicen que rectificar es de sabios y si algo me ha quedado claro es que este debate sí es ideológico la derecha tanto vasca como la derecha

no van a votar esto unos porque han venido a contarnos una teoría que a través de datos informes se puede interpretar como quieren que es el partido del gobierno y luego nos ha venido el señor maroto a hacer

de unas elecciones que vienen en mayo para contarnos una propuesta que ya conocíamos a través de los medios de comunicación

y usted ha venido a hablar aquí de algo porque a usted le viene bien pero es que no había propuesto nada

que hemos metido su enmienda literal lo que pasa es que usted quería

que desde luego yo no voy a entrar a hablar y usted hablaba de esos no y punto

y punto a utilizar este parlamento para lo que a usted le conviene y yo entiendo que usted es alcalde y no se puede separar de su nombramiento de alcalde pero aquí también es parlamentario y tendría también que velar por las políticas que salen del gobierno vasco que en ocasiones merecen ser corregidas y esta es una

hablando sí de los pensionistas pero usted sabe señor maroto que en la pobreza energética no solo les afecta a los pensionistas a algunos sí

y que tampoco recibe la rgi que están dentro de la pobreza energética

como no son pensionistas no le preocupan pues mire

han hecho una reforma laboral brutal hay unos salarios mediocres

no han subido las pensiones si todo eso estuviera un poquito mejor

que no estarían dentro de la pobreza energética y con la solución que usted nos propone aquí pretende cambiar la ley de euskadi porque no quieren cambiar lo que hacen en madrid

porque en fin usted tiene mucho que callar en este tema luego al señor carro decía

el principal factor de la pobreza energética es cómo está repartida la energía y el acceso que tienen los ciudadanos a la energía

quizás esto sería diferente porque el problema no es lo que usted nos plantea usted nos da datos que si europa que si en euskadi estamos mejor no mire es que este debate si ustedes se leen la justificación habla de pobreza energética entonces yo les pregunto qué quieren hacer ustedes con la pobreza energética

porque es que pueden ayudar ustedes pueden poner medidas en marcha para ayudar y entonces les dicen a aquellos

y usted señor maroto quiere participar de la política vasca en el parlamento vasco para ayudar a las familias que están dentro de la pobreza energética no le dice

y luego señor maneiro creo que después de haberle escuchado va a votar a favor

muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho por no decir con la mayoría entonces no entiendo que usted no participe de esto entonces me parece una vergüenza que ustedes vengan aquí y unos utilicen y otros utilicen otros cuando todos reconocen que el problema existe

otros acusan a los del gobierno vasco cuando la responsabilidad es suya oiga en fin

señor maroto cómo va a haber dinero para solucionar la pobreza energética si desde el gobierno de españa

de contradicciones por no decir otra cosa que nos lleva a dónde nos lleva y lo que no se puede hacer

con el invierno encima a utilizar excusas baratas para no poner soluciones sobre la mesa

sea probablemente el mejor que hay en españa de ayudas de emergencia social de renta de garantía de ingresos claro que sí pero es que todos hemos dicho aquí que es insuficiente

ni del gas ni del agua se pagan con la rgi porque no se puede porque tiene que modificar la ley

porque hay un montón de gente que se queda fuera del sistema y a esa gente qué le décimos que

pero lo que es una vergüenza es que es la décima vez que esto viene aquí la otra vez gracias a la ausencia de alguien salió a favor esta vez va a decaer la iniciativa

desde luego me parece una vergüenza que luego utilicemos los medios de comunicación

en fin creo que debieran mirar un poco dentro de sus propias ideologías políticas

y queda claro la derecha para lo que se une para lo que tiene que ver con el bolsillo

claro que sí claro señor carro que un planteamiento integral contra la pobreza

el problema es que parece que ese plan para luchar contra la pobreza no está dando sus resultados aquí en euskadi tampoco está dando sus resultados y no es que lo diga yo

cada vez más personas en pobreza cada vez más personas en riesgo de exclusión social en la comunidad autónoma vasca por lo tanto no es solo el tema de la pobreza hacer frente a la pobreza siendo esto importante pero es que además en ese ámbito los resultados y ante eso cada vez el sistema de protección es más débil también aquí porque decir que con la rgi o con las ayudas de emergencia social se puede hacer frente

de ser un error porque solo ataja uno de los problemas de la pobreza energética no es cierto por un lado porque ustedes no han hecho nada para

en la renta de garantía de ingresos los recortes que el partido socialista y el partido popular sí señor maroto el partido popular hicieron a la hora de cambiar de modificar la ley que regulaba la renta de garantía de ingresos

los requisitos de empadronamiento y reduciendo la cantidad total

un siete por ciento que hoy en día es ya más de un diez por ciento a la totalidad de las personas que cobran la renta de garantía de ingreso no solo a los pensionistas a la totalidad lo hicieron ustedes en la pasada legislatura qué pasa que una persona separada con cargas familiares que no sea pensionista

qué pasa que han hecho encuestas ustedes en vitoria y saben que son los pensionistas

por qué solo una subida de la renta de garantía de ingresos a las personas pensionistas y de quién y del partido que reformó la renta de garantía de ingresos

no es creíble señor maroto ninguna credibilidad ninguna credibilidad

y tampoco se puede llevar este tema por las ayudas de emergencia social

que presupuestó en el año dos mil catorce veinte coma cinco millónes de ayudas de emergencia social que fueron insuficientes y que los ayuntamientos tuvieron que cubrir

y ante esa realidad llegan los presupuestos del año dos mil quince

euros no está siendo suficientes las ayudas de emergencia social

por lo tanto es un error intentar atajar el tema de la pobreza energética solo desde el tema social pero es que además no lo están haciendo bien hay también que atajar desde el tema del modelo energético un modelo energético que ha encarecido en los últimos

un sesenta por ciento de la factura eléctrica mientras

el poder adquisitivo de las familias y de las personas bajaba por qué miramos a madrid por qué en su propuesta a la hora de atajar los problemas de ese modelo energético de esa reforma energética miran ustedes a madrid por qué nos dicen aquí

apelar al estado español al gobierno español y luego van ustedes a madrid y votan a favor de esa reforma energética ustedes votaron a favor

en madrid a favor de una reforma eléctrica que asegura durante los años de crisis

que tienen el oligopolio en el estado español ustedes votaron a favor de eso a favor de una reforma eléctrica que ha subido la factura en los hogares en más de sesenta por ciento en una situación de crisis socioeconómica

a madrid no desde aquí también se pueden hacer cosas y desde luego

de una ley que establece y que deja en manos de un oligopolio de empresas la factura eléctrica y todo el sistema energético de este país

sí gracias de nuevo señora presidenta señora rojo yo cuando digo que no voy a hablar de algo lo que hago es no hablar de eso ha dedicado

tres o cuatro minutos de sus cinco minutos a hablar de la propuesta del partido popular en relación a la modificación de la rgi para los complementos de pensiones

lo que sí he podido comprobar es que se lo saben ya bien y no me extraña porque es una propuesta muy sencilla es tan sencilla como decir que

con esos mismos fondos y sin subir los impuestos tal y como está proponiendo el pnv esos fondos se dediquen a ampliar los derechos y las coberturas de personas que necesiten de verdad la cobertura de la rgi y

discutir que hay más personas que lo necesitan los mayores con pensiones más bajas padecen la pobreza energética y es un hecho cierto y objetivo bienvenida

pensaba que los que el no y punto a discutir las propuestas de mejora en la rgi

en boca del señor andoni ortuzar y el consejero señor aburto

no y punto y tan claro como eso

no dicen que no y punto a lo que propone mi grupo ni a lo que propongo yo están diciendo que no y punto a una mayoría social que ustedes contrastan

señora rojo voy a tratar de explicarles una cuestión he insistido la propuesta que trae nuestro grupo aquí trata sobre medidas

ustedes plantean y sacan a colación en el debate las

no le veo el sentido de la sonrisa hoy al señor maeztu resulta que proponen las medidas para dar cobertura a las necesidades de la pobreza energética y mencionan las ayudas de emergencia social

qué parte de lo que estos señores están diciendo

si te he visto no me acuerdo no ha entendido bildu qué parte de

es decir cuando empieza el fresquito aquí en euskadi y después el frío y el frío duro de noviembre depende del año el de diciembre el de enero qué parte

si no está el ayuntamiento de turno poniendo después de sus recursos esas cantidades

que es un símil del no y punto qué parte no entienden porque la medida que ustedes proponen de las ayudas de emergencia social como manera de incrementar la renta disponible de muchas familias simplemente no les gusta a los señores del gobierno y aquí nadie fuerza al gobierno a que cambie su estrategia a mí me parece fundamental que si consiguiesemos en esta cámara que el gobierno vasco y el pnv dijera

tratar de demostrar un poco más de sensibilidad social en este momento con la que está cayendo vamos a cubrir las ayudas de emergencia social para todo el mundo los doce meses pero no cuando llega septiembre se corta el grifo y se acabó

no son la herramienta para favorecer una mayor capacidad en las rentas de muchas familias que padecen pobreza energética y entonces

llega esta propuesta la que la señora rojo se sabe de memoria que dice que no menciona y no hace más que subrayarla una y otra vez lo ha contado más veces que yo

y dado que nosotros tenemos un sistema propio y dado que en euskadi existe una ley que garantiza que las personas con pensiones bajas tienen un complemento de personas vía rgi

con una cantidad que podemos establecer que podemos debatir que podemos con datos con informes cuál es el problema para que esas personas no padezcan la pobreza energética simplemente con un apoyo desde los recursos públicos

cuál es el problema cuál yo no veo ninguno

la cerrazón ustedes y miro al conjunto del arco parlamentario se van a poner de moda en esta legislatura se van a poner de moda con tres palabras la de

a arreglar algunas cuestiones que son absolutamente básicas hoy

con el no y punto del pnv se ha sumado solidariamente la señora rojo

al jueves de hace dos semanas cuando decidieron a este debate nos lo quitamos de en medio salimos corriendo y damos una rueda de prensa después

o señor carro es un problema simplemente de lo que le parece a una mayoría social que paga impuestos y que quiere ser solidaria

pero evidentemente con políticas efectivas e inmediatas y la renta de garantía de ingresos aquí en euskadi es una herramienta inmediata de mañana para poder cumplir ese objetivo

y para el próximo año del dos mil quince contaremos con ciento ochenta y cinco millónes más de euros en nuestro modelo de protección social contaremos también

esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo por convicción señor maroto

dígale que usted va a transmitirle al partido popular que esa ley de pensiones que tiene la va a anular y le va a aumentar y van a tener por lo menos una pensión digna

o no y tampoco sé si en el caso de que saliera adelante este gobierno iba a cumplir este mandato parlamentario porque otros mandatos parlamentarios no han sido

es decir un grupo parlamentario cuando firma una transaccional con otro grupo parlamentario lógicamente tiene que medir los apoyos con los que cuenta con lo cual cada uno tiene que actuar según su responsabilidad yo señora rojo le dije si usted

original voto a favor de ella usted ha decidido votar o firmar una transaccional con otro grupo usted tiene que medir sus fuerzas nosotros
no podemos hacer más isiltasuna mesedez

de lo que hemos hecho votamos la iniciativa del pasado día veintisiete de febrero

firmamos una transaccional con ustedes y hemos trasladado esta condición

vasco como una condición presupuestaria ustedes sí pueden hacer algo más en lugar de lanzar soflamas ustedes pueden preocuparse más por los ciudadanos

ustedes pueden hacer algo más yo no puedo hacer más ustedes sí si les interesa tanto el asunto exijan al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco que incluya este asunto como condición sine qua non para apoyar y votar a favor de los presupuestos ustedes pueden hacerlo hablen de la renta de garantía de ingresos hablen de las ayudas de emergencia social

de un plan para luchar contra la pobreza y contra la pobreza infantil hablen de medidas especificas para luchar contra la pobreza energética hablen de esto

o no hay presupuestos ustedes pueden hacerlo porque tienen más parlamentarios que upyd a cada cual por lo tanto su responsabilidad

han incluido otra serie de asuntos ustedes habrán incluido

cantidades presupuestarias para determinados ayuntamientos del partido socialista esto es pensar en los intereses del partido socialista en lugar de pensar en los intereses de los ciudadanos todavía están a tiempo haga usted señora rojo menos caso al señor txarli prieto y haga más caso al conjunto de los ciudadanos el señor txarli prieto es solo uno y los vascos somos más de dos millónes por lo tanto

haga menos caso a lo que le ha dicho antes que me dijera usted a mí y haga menos caso ahora

y escuche haga usted caso si quiere si tanto le importa este asunto exija por lo tanto

que incluya medidas específicas para luchar contra la pobreza energética pero en realidad no les interesa este asunto usted firmó

voluntariamente para perder usted firmó esta transaccional para perder salvo que el grupo popular se abstenga o algún otro grupo que todo puede ser en todo caso como este gobierno no cumple los mandatos parlamentario lo importante no es lo que ocurra hoy

lo que ocurra en los próximos días en esa negociación presupuestaria a la que ustedes dan tanta importancia eskerrik asko maneiro jauna

queremos que tanto responsables políticos supuestamente contrarios a la violencia machista

cómo conjugan pronunciamientos a favor de la igualdad mientras con sus políticas aumentan las desigualdades sociales y de género frente a las que garantizan que las mujeres

y menos vulnerables somos conscientes que la mejora de las condiciones materiales aún suponiendo un gran avance no acaba con la violencia machista sabemos que existen mecanismos de socialización poderosos como las instituciones educativas los medios de comunicación

y también una la ideología del amor romántico que funciona como rodillo de diferenciación

que empuja a las mujeres a la abnegación fomenta que entablen o permanezcan en relaciones insatisfactorias se sientan menos si no tienen pareja u opten por la idea

es mejor a no tenerla si realmente los responsables políticos e institucionales se comprometieran de forma real y estructural en la lucha contra la desigualdad

pese a los discursos que la violencia machista se explica principalmente

este enfoque integral nos obliga a abrir un debate urgente sobre cómo nombrar la violencia machista quiénes la enfrentan sus formas analizar

las mujeres enfrentamos violencia machista en casa en la calle en el trabajo por parte de los hombres que a veces son parejas padres jefes profesores

o meros desconocidos pero también la sufren los cuerpos que desafían con su estructura biológica y su comportamiento sexual transexuales lesbianas homosexuales

o qué es ser mujer y por tanto desafiar el orden que legitima la dominación masculina indarkeria matxista salbuespeneko

eta jartzen da cuando hablamos de violencia no nos referimos a un único tipo de violencia hablamos de tres tipos de violencia la violencia directa

más fácilmente reconocible que acarrea daños físicos y emocionales podemos ver en las diferentes mujeres que han denunciado malos tratos o quienes han perdido la vida

en este sentido la precariedad económica y la feminización de la pobreza

para que muchas mujeres puedan salir de la situación de violencia machista que padecen estableciéndose un claro caso de violencia estructural en euskal herria

denuncias por violencia machista considerablemente en los últimos dos años y en tercer lugar la violencia simbólica o cultural

que existan la violencia directa y la estructural en la medida que hace que sean interpretadas consciente o inconscientemente como justas necesarias o inevitables como hemos dicho antes la religión el lenguaje los medios de comunicación

horretarako ezin gara geldirik geratu por todo lo mencionado anteriormente vuelvo a apelar a la responsabilidad política como institución que tenemos

en la enmienda de transacción que hay pactada porque supone situar a la violencia machista como lo que tenemos que hacer situarla en

orden que no puede esperar no solo los días

diario porque supone además para los grupos parlamentarios presentes un compromiso real y firme de trabajar para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad

de los hechos a las palabras en el parlamento vasco además nos da la posibilidad de profundizar en el conocimiento de esta realidad cómo funciona toda su dimensión

y también nos permite conocer políticas que se están desarrollando en otros países con importantes impactos positivos en la materia

el trabajo interinstitucional que se está realizando proponemos por ellos sumar esfuerzos sumarnos al compromiso y al trabajo que tenga un foco mediático es fundamental que tenga un tema de tal magnitud un foco mediático algo que

acertado y consideramos al contrario que somos conscientes de la posición privilegiada del parlamento para proyectar y difundir todo este trabajo que se debería de hacer con las puertas abiertas con luz y taquígrafos impregne todos los estamentos para que llegue al conjunto de la sociedad para mostrar nuestra responsabilidad política con la violencia machista para atajarla

fundamental además para dar pasos en el reconocimiento del movimiento de una vez por todas como sujeto político de pleno derecho en relación a la enmienda de transacción que plantean

voy a dejarla mejor para el siguiente turno

hacer una referencia y es que el gobierno vasco con sus políticas está dejando unas cifras verdaderamente alucinantes

en pasadas semanas del total de personas que están en riesgo real de pobreza el ochenta y dos por ciento son mujeres el setenta y dos por ciento del trabajo reproductivo y de cuidados

es realizado por mujeres ojo supone el veintinueve por ciento del producto interior bruto el ochenta y tres por ciento del trabajo a tiempo parcial es realizado por mujeres

euros por no hablar del irrisorio presupuesto de emakunde seis millónes de euros equivalente

nos parece que como mínimo tiene que contar con todos los recursos necesarios para atajar no solo la violencia machista sino transitar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria los sectores de servicios sectores completamente feminizados como la sanidad han sido los más

las trabajadoras del hogar quienes viven esclavizadas mujeres migrantes responsabilidad también del gobierno vasco por hacer caso omiso a las demandas de la asociación de trabajadoras del hogar en relación a la inspección de trabajo es absolutamente contradictorio hablar de género acometer brutales recortes que nos condenan a la miseria y a la precariedad

manifestando abiertamente que las mujeres no estamos entre sus prioridades los recortes presupuestarios recaen directamente en nosotras y nos abonan el terreno para vivir una vida precaria y esto es violencia machista esto es la violencia estructural de la que hablábamos y sino la atajamos
los hijos sanos del patriarcado seguirán acabando con nuestras vidas y seguirán matándonos eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea

gracias presidenta en fin nosotros no tenemos obviamente ningún problema en analizar las políticas contra la violencia de género

a diario sin embargo no veíamos y seguimos sin ver la necesidad de crear una ponencia para ello tal como nos proponía eh bildu y por cierto yo no dudo en que la totalidad de los partidos políticos vasco y este gobierno está

sensibilizado con esta cuestión esto está fuera de toda duda el gobierno hace todo lo que puede para acabar con esta lacra y todos los partidos políticos vascos también lógicamente hay cosas que mejorar y mucho que aprender y protocolos que poner en marcha

pero no se puede poner en cuestión la voluntad de ningún partido político vasco ni tampoco del gobierno para acabar con esta lacra que a todos nos preocupa ya digo que eh bildu nos propone una ponencia pero nosotros no lo vemos y el resto de partidos

existiendo emakunde creemos que es más correcto que el análisis de la eficacia de las políticas se ha coordinado por este

educación salud seguridad o justicia no vamos a decir eso de que si no se quiere tomar decisiones creamos una ponencia pero es que en este caso concreto

lo más efectivo y además nos parece que podría posponer en el tiempo unas modificaciones o correcciones de los protocolos y las políticas públicas que podrían servir

de muchas personas o para salvar la vida de muchas mujeres la violencia machista está claramente reconocida como problema social es una lacra para la sociedad en su conjunto y es un hecho que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres y es desde luego algo

a todos no únicamente a las mujeres nos atañe a las mujeres

de la sociedad cuando se ataca a una mujer cuando se asesina a una mujer nos atacan a cada uno de nosotros es un asunto que preocupa sobremanera

instituciones tenemos la ley orgánica uno barra dos mil cuatro de veintiocho de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género a nivel nacional tenemos la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero para la igualdad

tenemos planes elaborados y organismos específicos como el observatorio vasco de la violencia machista

en euskadi hay por tanto sensibilidad hay voluntad pero es obvio también que queda camino por recorrer y nuevas medidas de todo tipo adoptar las leyes aprobadas los protocolos puestos en marcha los organismos en funcionamiento los presupuestos destinados la movilización social son medidas

insuficientes ya que las cifras de víctimas por violencia machista no se han reducido significativamente en los últimos tiempos por lo tanto hay cosas mejorar efectivamente pero esto hay que hacerlo a diario todos los días del año hasta el día de hoy y durante dos mil catorce han sido asesinadas en españa cuarenta y cinco mujeres de las que solo habían denunciado catorce y de las que dos habían retirado la denuncia en dos mil trece habían sido asesinadas cincuenta mujeres

en los últimos tiempos solamente el dieciocho por ciento de las cuarenta y cinco mujeres asesinadas

alguna medida de protección una de esas cuarenta y cinco mujeres murió en el país vasco el día diecisiete de marzo fue asesinada

tenía treinta y cinco años estas cuarenta y cinco víctimas han dejado además treinta y dos menores huérfanos en euskadi en dos mil trece

treinta más que en dos mil doce treinta y tres mujeres han muerto en euskadi víctimas de agresiones sexistas durante la última década con estos datos no quiero deshumanizar el problema sino

pretendo señalar la gravedad del problema la violencia de género es una lacra social

para nuestra democracia por eso consideramos necesario tratar el asunto tantas veces como sea necesario evaluar las políticas realizar todos los análisis que se requieran reflexionar sobre la cuestión escuchar a los expertos aprender de lo que se hace en otros países para en última instancia

y perfeccionar todos los protocolos existentes para erradicar como digo esta lacra social y esta vergüenza pero euskadi ha sido pionera en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género por eso creo que debemos utilizar los efectivos de los que disponemos y reconocer también que aquí

el bagaje de emakunde y su conocimiento del problema y de las políticas y acciones que se han llevado a cabo al respecto supone una ayuda a la hora de evaluar la efectividad de las acciones llevadas a cabo hasta el momento por otro lado es imprescindible contar con la participación de los departamentos que están implicados que desde una perspectiva de género transversal deberían ser todos pero específicamente en lo relativo a los protocolos y según lo expuesto en el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico sexual concretamente algunos los relativos o los competentes en materia sanitaria en materia de seguridad ciudadana en materia de justicia en materia de servicios sociales

de educación como decía yo sí creo que el gobierno vasco está haciendo todo lo que puede y es sensible en relación a la lucha contra

de otras instituciones como el consejo general del poder judicial la fiscalía superior de la comunidad autónoma del país vasco las diputaciones forales el consejo médico vasco el consejo vasco

para remarcar que desde upyd consideramos necesaria una reformulación de la ley de violencia

incluyendo de este modo a otras víctimas como homosexuales niños ancianos personas con diversidad funcional

koldo losada presuntamente asesinado a manos de su marido este mismo mes en bilbao dando luz a los casos de violencia intragénero de la que no existen

y por supuesto seguir insistiendo en la educación y en la prevención hay cosas que mejorar y por lo tanto nuestra responsabilidad es intentar todas las medidas que se han puesto en marcha perfeccionarlas implementar todas las que sean necesarias porque este es un asunto que merece toda nuestra atención

es poco no podemos permitir que cada poco tiempo una mujer sea asesinada por violencia machista eskerrik asko maneiro jauna